de la ley tres barra mil novecientos ochenta y cinco del veintisiete de febrero por la que se crea y se regula la institución del ararteko ha designado ararteko

y para que conste y a los efectos de la publicación del nombramiento en el boletín oficial del país vasco la presente certificación con el visto bueno de la presidenta del parlamento vasco en vitoria gasteiz a dieciocho de febrero del dos mil veintiuno

de familias que no pueden permitirse satisfacer sus necesidades energéticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a hacer frente a este tipo de gastos

sufrir lo que se ha denominado como pobreza energética arazoa areagotu egiten da baliabide murritzekin eta bakarrik bizi diren pertsonez osatutako etxeetan

y por otro lado están también las aes el gobierno vasco tiene una partida de cuarenta y dos millónes

para ayudas de emergencia social que entre otros conceptos entre otros muchos incluyen también los gastos de energía debidos al suministro eléctrico de gas u otro tipo de combustible para uso doméstico son ayudas que pueden llegar hasta los novecientos euros anuales

aunque la situación no mejora la situación de las personas que tienen que solicitar esas ayudas de emergencia social porque no se han modificado las cuantías y porque los ayuntamientos ya venían incurriendo en ese gasto en esa inversión

las partidas destinadas a las aes que casi siempre se quedan cortas orain arte artikulatutako erantzunak ez nahikoak

kanpoan utzi dituzte datuek erakusten dute hori era argian los datos demuestran que no estamos solventando el problema las respuestas que se han venido articulando

a las situaciones de pobreza han estado limitadas a ayudas circunscritas a la disponibilidad

a los parámetros de las situaciones de pobreza real para entendernos que hay que ser muy pobre para poder acceder a estas ayudas

que está viviendo este tipo de situaciones que hemos descrito pero que no entran en esos parámetros tan estrechos de la pobreza los datos lo evidencian no sé a mí me suele gustar poner un ejemplo para ver si podemos entender de lo que

no todos los años son miles las personas que solicitan una beca de estudios de alojamiento de transporte evidentemente

a la educación se establecen unos criterios de ingresos máximos para acceder a las mismas pero no hay que ser pobre de solemnidad para acceder a una beca no hay que ser pobre de solemnidad las becas sirven para que

que están relacionados con la educación pues puedan tener unas ayudas que permitan esa igualdad de oportunidades no son más universalistas más ajustadas a cada una de las situaciones o necesidades

normalizadas y eso no pasa con las ayudas destinadas a paliar la pobreza energética esperantza egikaritzeko politika publikoen garaia dela uste dugu guk

energetikoak eskura eta bermatua izatea en definitiva lo que busca esta propuesta de ley

no pasar frío sea un derecho que se tenga garantizado el acceso a los suministros energéticos básicos

un sistema público para materializarlo y que todo ello se compatibilice con una transición energética acorde a la situación de emergencia climática que vivimos

es que lo que no es realista es pensar que se responde a este problema que hemos descrito con una partida de cuatrocientos mil euros eso sí que no es realista o con una parte

eso sí que no se corresponde con el principio de realidad sobre todo cuando esa partida por ejemplo la de cuatrocientos mil euros se mantiene inamovible en el tiempo

su insuficiencia lo que no es realista es pensar que haciendo lo mismo se van a conseguir objetivos diferentes

puede servir para decir que se hace algo pero realista no es lo que sí es real es que tenemos un problema gordo que es una experiencia vital que afecta

y que no se les da respuesta lo suyo no es realismo es dejadez y es incapacidad legeak

beneficios record ha ganado ocho veces más que el año anterior ganancia record también para iberdrola ha ganado un cuatro coma dos por ciento más este año

es obsceno y no podemos aceptar que esos beneficios indecentes se sitúen por encima del bienestar de la ciudadanía no lo podemos

que es posible la aplicación de una política propia de bienestar social que sea eficaz para el objetivo último de ayudar a los colectivos más desfavorecidos

comercializador en las afecciones que ya tiene establecidas al atribuirse al bono social la naturaleza de obligación de servicio público como se nos señala

porque hay algo que no cuadra igual es que no es posible son ustedes como el perro del hortelano

lo hago aquí mismo desde el escaño bueno en primer lugar buenos días a todos

leyes que son irrealizables qué buscan con este tipo de iniciativas ir de salvadores marcar perfil de izquierda porque se puede ser de izquierdas

nosotros creemos que esto es producto de una ideología sectaria y reaccionaria a toda máquina lo que buscan no es una solución de lo social sino

el contexto energético es muy complejo y ustedes lo saben los sectores eléctricos y de gas tienen sus propios derechos y obligaciones establecidos a nivel jurídico

los impuestos lo que tenemos claro es que menos impuestos y menos demagogia sería la fórmula correcta gracias eskerrik asko martínez andrea

buenos días muchas gracias presidenta señorías

de esta proposición de ley porque vamos a ver el fin creo que es compartido por todos que todas las ciudadanas

y ciudadanos que viven en la comunidad autónoma del país vasco tienen que tener acceso a los recursos energéticos básicos que les proporcione un nivel de vida de calidad lo compartimos todos los aquí presentes creo nadie se niega a esta afirmación es el objetivo de la labor política

pero la proposición de ley que ustedes han presentado tiene más posibilidades de ser debatida como una proposición no de ley porque ustedes aquí hacen declaraciones de intenciones

y existe otra manera de paliar las dificultades de las familias con respecto al bienestar energético

gestionadas por los ayuntamientos que podemos debatir en un momento dado sobre las ayudas de emergencia sobre la falta

económicos pero ustedes aquí quieren desarrollar una ley escudándose en la búsqueda del bienestar

hacen en esta proposición de ley es instar al gobierno a desarrollar

con el objetivo de garantizar el suministro de energía en un uso térmico entre los dieciocho y los veinticinco grados y esto se podría

porque de verdad entendemos el fin lo podemos compartir lo compartimos

este dilema moral entre subvencionar a estas superempresas con beneficios record

en pobreza en situación de pobreza energética que estas empresas suban

mientras los niños y las niñas están haciendo los deberes con guantes en sus casas porque pasan frío en el oasis vasco hace mucho frío en definitiva creemos

a empresas a multinacionales energéticas que por otra parte sirven a través de las puertas giratorias para colocar

tanto del pnv como del psoe este oligopolio energético

frente a esta actitud yo creo que es responsabilidad del gobierno precisamente el bienestar energético de la ciudadanía y esta garantía bien merece una ley y un debate en este parlamento eskerrik asko

interbentzioa egingo dut es evidente que tanto la pobreza energética

democratizar y abaratar el coste de la energía además de potenciar el empleo de energías limpias son elementos importantes en el debate político social y económico actual el plan de recuperación transformación y resiliencia españa puede y el propio plan euskadi next son ejemplos sucesivos de cómo intentar aprovechar y concretar los ahora ochenta mil millónes de euros previstos en next generation como subvenciones a fondo perdido

para euskadi una parte de ellas como primera conclusión parece claro que la proposición de ley pretende captar parte de la rabiosa actualidad que nos toca enfrentar pero rápidamente rebaja las expectativas porque no se molesta en profundizar en el contexto real de ahora mismo el estado de la cuestión

y esa falta de profundidad en el análisis termina inutilizando sus propuestas en un contexto con muchos cambios sustantivos ya en marcha y con mucho dinero puesto a disposición

llama poderosamente la atención que toda la exposición de motivos aproximadamente trece hojas más de una tercera parte del texto de la propia ley no se ha hecho referencia en ningún momento a las medidas que actualmente ya existen para la lucha contra la pobreza energética a nivel europeo eficiencia energética rehabilitación

comercializadoras y también el autonómico en cuanto a

aes por pobreza energética aunque busquemos soluciones simples

contextos que son francamente complejos en la actualidad el gobierno vasco ya tiene establecidos cauces de ayudas y protección para la ciudadanía en riesgo de padecer pobreza

de energías renovables políticas bidireccionales podríamos decir que en todo caso son políticas activas ya en marcha que cubren el objeto de la presente proposición esta propuesta de ley pretende establecer un sistema de prestaciones para el bienestar energético de dos tipos económicas y tecnológicas y dice que serán compatibles con el resto de ayudas

inmediatamente es necesaria realmente una ayuda nueva o con el bono social

ya estamos asegurando un buen nivel de protección y se trataría por tanto

la respuesta insistimos es que en su definición y alcance actual la proposición de ley actual no aporta nada nuevo que aporte valor a lo ya existente finalmente la normativa estatal ya regula el tema de los cortes de suministro las obligaciones de las empresas comercializadoras etcétera dudamos que una normativa pueda intervenir en esta materia teniendo en cuenta que las competencias son propias del estado desde el punto de vista de la técnica normativa es una normativa deficiente lamento decirlo

está el contenido impreciso lleno de conceptos sin definición preceptos que son declaraciones de intenciones sin mensaje normativo no se diferencian adecuadamente

ayuntamientos importantísimo en este caso diputación gobierno vasco salvo que el último es el que precisamente financia todo esto

el incumplimiento del principio de cautela por parte de cualquiera de las partes dice la ley o la proposición de ley lo cual es genial porque no se sabe en qué consiste el principio de cautela y sobre las partes se suscitan serias

lavar y planchar la ropa o solo la temperatura porque este proyecto de esta proposición de ley precisamente

la propuesta asigna a la competencia de los planes de rehabilitación al departamento competente en energía obviando al de vivienda y la inspección

entendemos que esta proposición de ley cuando menos es absolutamente errónea en su concepto en tanto en cuanto deja fuera de departamentos del gobierno vasco que precisamente son los que deben de gestionar

en definitiva redactar la norma es un trabajo difícil muy difícil pero es el último y debe de acompañar con éxito los trabajos de análisis y contexto previos que lamento decir que en el caso de esta proposición de ley

erabat zeharkakoa da para acabar con la pobreza hay que crear empleo empleo de calidad

en la medida de todas nuestras posibilidades todos hemos de cambiar algunas cosas

así como por qué no implementar otro tipo de empresas y proporcionar acceso a la riqueza a todos los vascos y vascas en especial los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad así mismo y con una visión transversal en materia de energía en relación a las viviendas tenemos que seguir mejorando la eficiencia energética de las mismas no nos ha gustado esta proposición de ley

y lo décimos sin ningún ánimo de ofender ni en la forma

por lo que respecta a la forma y comenzando por el principio creemos que se han utilizado a menudo y extrapolado datos de nivel

de que no son extrapolables y en cuanto al contenido hemos concluido que en nombre de la pobreza energética y el derecho subjetivo en torno a la misma

e introducir un determinado modelo modelo que por una de sus banderas lleva por ejemplo el autoconsumo tal vez el autoconsumo sea el futuro lo que hay que fomentar

no habremos acabado con la pobreza energética luego no daríamos con la herramienta para atacar el objetivo que creo que todos pretendemos así mismo nos ha parecido contradictorio con respecto al efecto invernadero cuando se quiere establecer el derecho a vivir en las viviendas una temperatura de entre dieciocho y veinticinco grados a pesar de que en esta tribuna se ha establecido el dieciocho veinte o en el régimen sancionador cuando como única infracción grave se establece el no cumplir el principio de cautela

a la hora de decidir si se ha cumplido o no tal principio deigarri egin zaigu bestalde lege proposamenean agertzen ez dena gaiaren adituak ez garenok ere

un maltrato institucional al que han estado sometidas las trabajadoras las personas residentes y sus familias

azken bururaino eramaten dutena un modelo en el que aflora la desigualdad territorial y no solo está afectando a la atención residencial sino que está contribuyendo a una gran desprotección social y encima bajo la sospecha

por muchas noticias esperanzadoras que haya sobre la vacunación que ha sido un éxito el descenso de contagios el anuncio del cien por ciento de la vacunación en residencias el problema aún no está resuelto hay otras noticias a las que no estamos prestando mucha atención o por lo menos desde el gobierno no se les presta la sospecha de que no se ha conocido la dimensión real del problema

hobeto esan izan ditugu eta aldundien esanetan ordea mila hamar las disparidades en los resultados de las encuestas de satisfacción

o si las hacen las asociaciones de familias las huelgas de las trabajadoras del sector

salir de la lógica de la inmediatez y de la urgencia y tenemos que atrevernos a abordar el debate real el que queda siempre postergado la reorganización

incluido el sistema residencial y todos los contemplados en el decreto de cartera esta reorganización tiene que responder a un modelo de país que dé cohesión social y territorial porque hay ausencia de modelo común tres territorios tres modelos honetan ere

bat bakarra eta bera ona lo que toca ahora es que el gobierno vasco lidere tiene que rendir cuentas y evaluar

interdepartamental e interinstitucional porque cuando hablamos de éxito

lo que estamos hablando es de justicia social otsailaren hogeian gogoratu genuena gizarte batek bere erakundeen bidez bere buruari ematen dio justizia da porque hacer políticas de cuidados es reconocer a la práctica

uno de sus aportes fundamentales que capital y vida están en conflicto que los cuidados son

y que no se puede seguir descansando sobre las familias sobre los cuerpos de las mujeres la responsabilidad de los mismos por lo tanto

es una tarea que no podemos permitirnos el lujo de postergar beraz garaia da luzamendu eta atzerapenik gabe zaintzak

gure bizkar eta bizkarraren gainean hartu es por ello que desde elkarrekin podemos izquierda unida traemos en esta moción propuestas muy claras y concretas que se haga una investigación general y se depuren responsabilidades

porque está más que probado que se han incumplido normativas y protocolos en las residencias

porque el gobierno vasco debería ser el primer interesado en esclarecer hechos en investigar en promover estas inspecciones porque es la forma en la que conseguimos legitimidad democrática damos certezas y demostramos que somos tan responsables como le pedimos a la ciudadanía

que se dote a la dirección de la alta inspección en materia de servicios sociales de recursos económicos y personales y que cumpla con las funciones atribuidas como es la de velar por el cumplimiento de las condiciones que garantizan el derecho a los servicios sociales la adecuación del nivel de servicios y prestaciones

o que emita un informe para su remisión a esta cámara otra de nuestras propuestas es que se haga una auditoría independiente de los centros residenciales

vienen criticando reiteradamente el hecho de que las diputaciones se inspeccionen así mismas y en muchos casos se duda también si es que lo hacen esto no da confianza a la ciudadanía tumban con sus rodillos en juntas generales toda iniciativa de la oposición que vaya en este sentido

o en juntas de araba recientemente y esto genera mucha sensación de desconfianza

y es fundamental evaluar desde una perspectiva integral también proponemos que se cree un espacio de participación con los agentes sociales con los sindicatos con las asociaciones de familiares y usuarias incluso con las propias usuarias llevamos

que no se reúnen con ellas que no escuchan sus aportaciones que tampoco hacen caso a sus reivindicaciones laborales reivindicamos

auzolana eta bertan gozo ez dira bateragarriak esa es la diferencia entre la gobernanza que mejora las condiciones de vida y un gobierno desde despacho otra de nuestras propuestas es que se diseñe una campaña de sensibilización una campaña diseñada

para informar de los protocolos la prevención de riesgos la vacunación también proponemos que se forme al personal de las residencias que se les forme y para la correcta implementación y seguimiento de planes

creo que la lógica de nuestras propuestas es muy clara si la ciudadanía si las trabajadoras de las residencias si usuarias y familiares no conocen sus derechos

de terceros o lo que es lo mismo las dejamos sujetas a la precariedad y a la desinformación nuestras propuestas repito son claras son sencillas y además entran dentro del marco actual que manejan y supondría

porque lo que ahora impera es la descoordinación la desinformación y la desprotección que todo ello genera eh bilduri

van en línea con las nuestras aunque no firme nuestra enmienda sé que en el tema de hoy tenemos alguna línea común y quería agradecerle eaj

arautzen dituen dekretua egokitzea bueno no obstante pues me gustaría pedirles que reconsiderasen su postura

porque bueno yo creo que asuntos que recogemos en nuestra moción

del marco legal que establece el gobierno vasco por otro lado también me parece cada vez más evidente su intención de no moverse ni un ápice de enrocarse

de la ciudadanía en este caso del sufrimiento de la gente de las residencias

y bueno me parece que enmiendan iniciativas de la oposición

desde mi grupo parlamentario desde elkarrekin podemos izquierda unida no vamos a renunciar a la utopía porque además esta utopía cada vez es más real y esta utopía se llama cambio de modelo residencial les pido por favor que no dejemos pasar lo que a todas luces ha sido un duelo real lo que ha sido un duelo comunitario sin que las familias y las usuarias

no podemos permitirnos otra década desaprovechada y yo creo que se lo debemos a todas nuestras mayores y que con mociones de este tipo podemos hacer

garrantzitsu bat duela irtenbideak bilatzerakoan eta martxan jartzerakoan bueno el debate de la situación de las residencias no es nuevo en euskadi y en este parlamento lo hemos tratado en numerosas ocasiones como señalaba a veces ha sido posible amplios otras veces no han sido posibles esos acuerdos con tanto consenso pero sí por lo menos en algunos puntos dejando

los diferentes grupos planteamientos más partidistas de lado hemos hecho posible acuerdos

en la comunidad autónoma del país vasco si bien la gestión de estos centros

los servicios sociales sí que el gobierno vasco tiene unas competencias atribuidas en la ley de servicios sociales dos mil cinco y en muchas ocasiones

la falta de diligencia o la falta de liderazgo por parte del gobierno vasco a la hora de desarrollar los instrumentos

que además fue una figura que introdujimos nosotros en el debate vía enmienda de esta ley hace ya como digo unos cuantos años y

no sea ejercida como tal por parte del gobierno vasco en ese sentido es una de las cuestiones que planteamos en nuestra enmienda de totalidad que presentamos en la iniciativa de elkarrekin podemos eta uste dugu eskumen hau

eusko jaurlaritzaren eskumena dela por otra parte como también hemos reiterado por parte de este grupo en algunos otros debates que hemos tratado sobre el tema de las residencias y su situación y los problemas algunos como decía que ya

de forma estructural pero otros que también han aflorado de forma más evidente con la crisis de la pandemia a la hora de gestionar estas situaciones

material de protección al personal de las residencias me estoy acordado también de la elaboración de protocolos que llegaron un poco tarde un poco la situación de desamparo en la que

residenciales y que aunque luego sí se pudo encauzar la situación arbitrando los instrumentos también

dar una solución a las situaciones que se planteaban en el día a día de las residencias pues como digo creo que por parte del gobierno vasco se podían también haber hecho

algo que también es reiterativo en este parlamento ya alcanzamos un acuerdo en su momento amplio en este parlamento en relación a la revisión del decreto de centros residenciales y creo que es hora tenemos además aquí a la señora consejera que el gobierno

una sensibilidad en torno a esta cuestión y aparte ella misma también se ha comprometido a abordar

es importante analizar la situación de las residencias

conveniente que se haga un análisis exhaustivo de la problemática las deficiencias que se hayan podido detectar y por otra parte también apoyamos la elaboración

nos marque el camino a seguir en relación a qué medidas son necesarias para como digo paliar y subsanar muchos de los déficits detectados bueno en definitiva se me dio también la oportunidad

cuestión en el texto que finalmente han suscrito bildu y podemos alguna aportación bueno yo en ese sentido

en el que estamos en común y recoge los planteamientos que hemos planteado desde nuestro grupo apoyaremos la enmienda de transacción acordada por el grupo

testigantza honela dio prefería muchas veces que los mayores mientras no hubiese resultados fiables de las pruebas quedasen encerrados en sus habitaciones

una sucesión de puertas cerradas en ocasiones con llave y personas golpeando y suplicando por salir un horror

pero el problema no es que no tenga que ver el problema no es que los testimonios recogidos aquí no formen parte de nuestra realidad el problema

relato de su relato azken asteetan eta hilabeteetan

gainera ikuskapen akta horretan irakurri daiteke hitzez hitz en la habitación número cinco se encuentra un usuaria covid diecinueve confirmada

hablar en tono de voz alto y gritar refiere la cuidadora que es habitual egun bat beranduago

edo irakurri dezakegu una de las personas que ha dado positivo es deambulante y de trato difícil en el momento de la visita oímos cómo golpea la puerta en repetidas ocasiones bueno jarraitu dezaket baina hauek errealitate horren bizitako

tribuna honetan bizipen pertsonalak politikoak ere badira existe una conexión íntima entre los problemas personales y los problemas

que es atada contra su voluntad o una persona que se encierra que grita y que no entiende nada es también un problema político

de los datos también podemos extraer información y conocimiento qué nos dicen los datos por poner unos ejemplos que en la primera ola por ejemplo

centro residencial gestionado por una gran multinacional donde en apenas unas semanas una cuarta parte de los usuarios fallecieron al menos la mitad con covid positivo confirmado también en la primera ola por ejemplo en bizkaia

se contagiaron y al menos la mitad fallecieron en el lapso de pocas semanas

en un centro en la tercera ola insisto en un centro de ciento tres usuarios se

noventa y tres y un número importante falleció podría seguir no quiero dejar de mencionar los datos sin comentar el último enredo estadístico

de salud y el viceconsejero quintas respondió no voy a entrar en la respuesta de si son quinientos o mil pero hay una cuestión de la respuesta que dio el viceconsejero que sí que me parece subrayable dijo

que contradigan a las cifras de las diputaciones forales y ahí está la clave

de toda la pandemia el verdadero hecho diferencial vasco en la gestión de los centros residenciales es no haber intervenido

pero para no intervenir necesitamos una justificación necesita una justificación y ahí caemos en el relato

es conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho conocimiento general de un hecho

o cuento el problema es que se está utilizando esta segunda acepción

algunos ejemplos de relatos de cómo se construyen relatos pero no lo haré lo haré tal vez en la réplica todo por el relato

les insistía estamos sufriendo un fenómeno de relato hay que ser honestos con el relato si ha pasado

más primera acepción de relato y menos segunda acepción más conocimiento y menos cuento hay que ser honestos honestidad en el relato honestidad en el relato de lo ocurrido es lo que pedimos hoy aquí

queremos saber queremos saber qué quiénes cuándo dónde y sobre todo por qué

zeintzuk diren erantzunak eta erantzun horiek ez dituzuelako gustuko la clave yo creo que consiste no tanto en las preguntas

prever no nos hagamos preguntas cuya respuesta pueda incomodarnos eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta hoy debatimos sobre medidas urgentes para garantizar la efectividad y adecuación de los protocolos del covid diecinueve en los servicios sociales residenciales pero luego

que el grupo proponente incluye en su propuesta en esta moción y lo que vemos es que la intención no tiene mucho que ver con el título planteado

es otra manera de presentar ante esta cámara su verdadera intención que es que se lleve a cabo una investigación general del estado

vamos a hacer un poco de historia ustedes el grupo parlamentario elkarrekin podemos señora gonzález iniciaron el uno de octubre en este parlamento vasco el debate sobre una propuesta planteada para que se procediera a crear una ponencia sobre el sistema

en aquel momento esta propuesta no prosperó pero salió aprobada una enmienda transaccional

populares vascos ciudadanos y dentro de esa enmienda transaccional entre otras cosas se recogía ya la necesidad y compromiso de llevar a cabo la modificación del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve de centros residenciales compromiso que

dentro de ese acuerdo de gobierno así como también dentro de este acuerdo de gobierno está asumido el compromiso de abordar la revisión del modelo de cuidados en un sentido amplio también en otro de los puntos se señalaba y se hacía referencia y se instaba al gobierno vasco a que a través de la estrategia de personas cuidadoras no profesionales

y cronograma de actuación y presupuesto necesario para ello es decir ya contemplaba el compromiso de hacer el análisis de esta situación actual es por ello por lo que no estábamos en aquel momento de acuerdo con la necesidad de contar con una ponencia de cuidados dentro de este parlamento y llegamos a esta iniciativa

se debatió en el pleno del cinco de febrero previa a la moción que hoy debatimos y de repente también

se presenta otra iniciativa por los parlamentarios y parlamentarias del grupo eh bildu donde se propone también la creación de una comisión especial de estudio que parta de una auditoria de todos los centros residenciales crisis del covid diecinueve y realice en el plazo de seis meses un dictamen de conclusiones que se tendrá

dentro del decreto ciento dieciséis barra dos mil diecinueve de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco

lo que quieren ustedes es que se inicie una investigación general del estado actual de las residencias no para debatir sobre el modelo que queremos o no

incumplimientos de normativa y protocolos y se depuren las responsabilidades caso de que se detecten

piden reforzar la competencia de la alta inspección

de de la alta inspección y claro en la enmienda a la totalidad planteada por el grupo eh bildu ante la iniciativa que se debate hoy qué es lo que hacen pues recoger todas las acciones que ya presentan en la pnl que presentaron ellos el cinco

sino pedir el aumento de la alta inspección de educación y ambas lógicamente se han plasmado y se han unificado en la enmienda

el grupo elkarrekin podemos y el grupo eh bildu y que parece que apoyará el grupo popular ciudadanos es decir lo que quieren ambas iniciativas es que se decida dentro de este parlamento

residenciales es decir sustituir el trabajo que debe realizar el propio gobierno vasco decidiendo aquí que quieren que se entre o no y aparte de iniciar una comisión de estudio o de investigación que es la finalidad perseguida desde el principio

por el propio gobierno vasco en el ámbito de las residencias de personas mayores

nosotros no estamos de acuerdo con la política de determinados grupos de la oposición que lo que quieren es sembrar la duda

de investigación para depurar responsabilidades porque eso es lo único que en definitiva

les interesa pero ustedes no tienen en cuenta

del gobierno vasco durante este último año desde el inicio de la pandemia y entre esas medidas destaco como una de las medidas adoptadas y que ha servido para mitigar las consecuencias de la pandemia de covid diecinueve

y la coordinación que se ha producido en todo momento desde el ministerio de políticas sociales con el gobierno vasco desde el departamento de salud y el de igualdad justicia y políticas sociales y las diputaciones forales haciendo frente con la misma

muy grave aunque ustedes señora gonzález lo pongan en duda y además para presentar esta iniciativa ha utilizado usted los datos del informe de médicos sin fronteras que se elaboró en agosto del dos mil veinte para toda

ya hace referencia como señaló la señora consejera en su intervención del cinco de febrero a que los mecanismos asistenciales han funcionado en euskadi y que se ha hecho un gran esfuerzo dentro de las residencias de euskadi con el fin de implementar

y las medidas de prevención y control y han percibido una mayor fluidez en esa coordinación cosa que no han visto en otras comunidades autónomas

eso dentro de su intervención y además olvidan también que son las diputaciones forales las que tienen la competencia directa en la gestión de los centros pero se lleva a cabo una coordinación sanitaria para paliar los efectos y además

la consejera artolazabal en su intervención del cinco de febrero se adoptaron muchas medidas se aprobaron planes de contingencia

cumpliendo con las recomendaciones de ese informe precisamente se ampliaron los equipos de inspección de centros residenciales con la participación de personas

de políticas sociales es decir se hizo ya un refuerzo de la actuación

aparte de otras muchas más medidas y además se adopta tanto en el acuerdo de gobierno como en la enmienda transaccional ya aprobada el uno octubre el compromiso de modificación de este decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve y hay un compromiso ya de que se va

los ratios y se va a realizar también una revisión del modelo de residencias con la provisión de este servicio

a la vacunación de los residentes mayores y de los profesionales que prestan servicios de las mismas lo que va a servir también para estar en unas mejores

a futuro y por todos estos argumentos no podemos estar de acuerdo con la iniciativa planteada porque consideramos que no es necesaria esa comisión de estudio e investigación la revisión del modelo es un compromiso que ya se ha asumido

realizando tampoco estamos de acuerdo con la enmienda del grupo popular ciudadanos que vuelve a pedir de nuevo la necesidad de modificación del decreto de residencias y ese compromiso ya asumido y por lo tanto lo que vamos a apoyar es nuestra enmienda

vascos y socialistas vascos porque en definitiva recoge el compromiso que ya asumimos dentro

bilatzea ez seguimos en la lucha de modelos maquillando las iniciativas con otro tipo de supuestos objetivos

la coordinación y la colaboración entre el gobierno vasco y las tres diputaciones forales ha sido sigue siendo y seguirá siendo constante y siempre en pos de unos cuidados y una atención de carácter integral

teniendo en cuenta que no ha habido ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con los grupos que apoyamos al gobierno y he dicho intención no intento intención porque si por intención se considera enviar un texto que engloba todas las enmiendas de los grupos menos la nuestra

que engloba todas las enmiendas de los grupos menos la nuestra pues desde luego me parece una manera cuanto menos curiosa de querer llegar a un acuerdo dejando de lado directamente

y me parece que mediante esta moción se quiere dejar muchas cuestiones como en entredicho o cuestionarlas directamente por una parte se pide valorar si la gestión

sin duda durante esta pandemia todos y todas hemos ido aprendiendo sobre esta materia a partir de la experiencia y sin duda también es necesario consolidar esta experiencia y reforzar la capacidad del sistema y de cada uno de los centros residenciales con diferentes relevantes relevantes cuestiones como pues la ubicación

para responder a situaciones como esta u otras que puedan darse en el futuro pero para hacer bien esta tarea consideramos que es importante en nuestra opinión

diferenciar aspectos y tomar en consideración múltiples factores como he dicho anteriormente además de la gestión de cada centro enriqueciendo el análisis

en relación con aspectos como la calidad de la gestión de los centros u otros como por ejemplo el modelo de gestión pública directa o privada concertada

estrecha hasta el punto de establecer una conexión directa

como responsables de la gestión de los centros residenciales para las personas mayores integrados del sistema vasco de servicios sociales y también como responsables de la inspección

desde el primer momento se aprobaron planes de contingencia se ampliaron los equipos de inspección de centros residenciales tanto los servicios forales de inspección

hasieratik y en ese marco se han desarrollado también inspecciones conjuntas por parte del departamento de salud y las diputaciones forales en los centros y es que las competencias del gobierno del departamento

no incluyen la inspección de centros de acuerdo con la ley es a las diputaciones forales a quienes compete la inspección de los centros tanto autorizados como homologados y en caso de identificar incumplimientos de la normativa y protocolos adoptar las medidas pertinentes en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con el régimen infracciones y sanciones establecidos en la ley

bertako gizarte ekintzako teknikoek egindako informea informe coordinado por el servicio de inspección y control y el servicio de centros del departamento

arloko inspekzioagaz beraz actuaciones pues creo que hay

quería decirle a la señora sánchez del psoe que

qué es lo que tienen que hacer porque lo tienen acordado en el acuerdo de gobierno porque lo suscriben en las

nosotras lo único que les pedimos es que lo cumplan yo creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo si ustedes saben lo que tienen que hacer

firmando y reafirmando continuamente aquí y no lo hacen pues desde algún grupo político tienen que decirles que se muevan que está muy bien firmar un acuerdo de gobierno hace cinco meses que está muy bien

ustedes mismos para sí mismos pero habrá que cumplirlas en algún momento habrá que empezar los datos que manejamos son los mismos las fuentes los datos del informe de medicus mundi el de médicos sin fronteras esos datos son los mismos

he denunciado aquí es que los datos que vienen de las fuentes públicas no son los mismos y eso

el sistema de cuidados siempre voy a recordar ese pleno todas estaban a favor pero luego no votaron a favor porque el sistema replantea un sistema de cuidados

eso sí que es de justicia social es que qué es lo que estamos viendo qué es lo que estamos viviendo

educativo lo estamos viendo en los servicios sociales lo estamos viendo en la atención primaria es que repensar el sistema de cuidados es que es algo urgente es urgente

yo creo que nosotras no maquillamos las iniciativas

en la exposición cierto es que nosotras lo que queremos es cambiar el modelo residencial

porque igual si quisiesemos seguir en el modelo que tenemos igual pues no estaríamos sentadas ahí estaríamos sentadas de este lado entonces no creo que maquillemos yo creo que somos muy claras somos muy sinceras

y bueno y aprender de la experiencia ha mencionado usted tres olas hemos tenido

de personas muertas en residencias estamos viendo continuamente las huelgas de las trabajadoras de las residencias eso alguna experiencia de ahí hay que sacar algo porque no sirve que ahora volvamos otra vez y digamos no es que otra vez ahora es la variante es la variante de no sé dónde claro no tenemos experiencia con esto pero si es que en gestión está casi todo inventado

y no dejar pasar el tiempo porque ahora mismo el tiempo es muerte para tomar distancia que también ha dicho

investigaciones independientes porque inspeccionarte a ti misma que es lo que estábamos hablando lo que hacen las diputaciones

investigarse a sí mismas hay que buscar un ojo externo un ojo externo que ponga un poco de distancia un poco de equilibrio

nosotras yo creo que también pedimos algo clarísimo y

liderazgo somos conocedoras de las competencias que tienen las diputaciones y de las competencias que tiene el gobierno vasco y lo que no vemos es liderazgo se lo decía a la consejera en una interpelación el otro día que desde los servicios sociales desde las políticas de servicios sociales se podría tener muchísimo más liderazgo del que estamos viendo en lo que estamos viviendo

incluso me atrevería a decir que casi tanto como en sanidad

y en este caso lo que le estamos pidiendo al gobierno vasco es liderazgo y les pedimos unificar criterios tres territorios tres modelos

cada uno tendrá cosas buenas saquemos las cosas buenas que tienen

las propuestas de elkarrekin podemos izquierda unida yo creo que tienen valor político y tienen valor político porque tienen valor humano eskerrik asko

andrea zure baimenarekin eserlekutik egingo dut erreplika hau bueno las cifras yo creo que hablan por sí mismas no casi

en el año dos mil veinte en los centros residenciales el cuarenta por ciento de las muertes fallecimientos que se producían en el país vasco en relación a la pandemia se producía en centros residenciales y de ahora pues más de mil personas han fallecido

eso yo creo que obliga a las instituciones públicas a las diferentes instituciones públicas a hacer una reflexión qué ha podido suceder en los centros residenciales en la gestión

que el gobierno vasco aunque las competencias en la gestión de estos centros corresponde a las diputaciones forales el gobierno vasco sí tiene competencias tiene competencias normativas

hay que recordar que la diligencia del gobierno vasco en esta materia ha brillado por su ausencia en lo que es

sucesivos decretos que se derivan de la ley de servicios sociales del año dos mil cinco y otra de las cuestiones pendientes es la alta inspección esta es una figura que fue recogida ya lo dicho antes a propuesta de nuestro grupo en esta ley y el gobierno vasco

que por decírselo a la portavoz del partido nacionalista vasco yo creo que sin perjuicio de las competencias de gestión propias que corresponden a las instituciones forales

de inspección que tiene que ejercer y por lo tanto no se puede escapar de las competencias que legalmente le atribuye la ley y eso es un poco lo que estamos

debates y es lo que plasmamos en esta enmienda ustedes también en su enmienda hablan del propio decreto de centros residenciales es decir tiene una capacidad normativa

parlamento vasco estas cuestiones y por lo tanto creo que uno no puede

es lo que estamos reclamando el gobierno vasco que haga que asuma su responsabilidad

decía antes en mi primera intervención que algunos ejemplos de cómo se está construyendo ese relato se pretende construir un relato

en la segunda acepción del término que es como cuento no como análisis objetivo de la realidad

antes hablaba de un centro de la tercera ola de que en

recientemente el cien por ciento de

pues a pesar de eso la consejera el pasado día cinco nos decía literalmente

realidad relato algo similar pasaba cuando también la consejera era entrevistada el veintisiete de abril en el correo pueden

y manifestaba que el modelo había protegido a las personas el modelo residencial porque habían fallecido quinientos personas

que el modelo había protegido el cinco de febrero cuando ese número de fallecidos ya se ha duplicado y ha superado al menos mil

modelo válido para proteger a las personas sostener ese relato sostener ese relato en contra de la realidad en contra de la realidad

durante el pasado debate presupuestario se habló en múltiples ocasiones de

hoy cuando mi grupo en la aportación a este debate la aportación fundamental que hacía

no pedimos algo que no se hiciera en nafarroa esta auditoría

en los centros residenciales esta auditoría se realizó después de la primera ola

para con una serie de conocimiento y extrajo una serie de conclusiones que implementaron en los centros durante la segunda ola no pedimos nada más que esto y hablar de nafarroa también me permite hablar del decreto

que ya aunque se publicó en septiembre y nunca llegó a estar en vigor todavía hoy no está en vigor ese decreto no tiene plenos efectos

que se revisara porque había elementos pues francamente inaceptables en cuanto al modelo que se planteaba ha

se pregunta y se nos responde que bueno pues que están pendientes de iniciar ese proceso de iniciar ese proceso de esa

mientras tanto vuelvo a nafarroa y entre la primera y la segunda ola echaron a rodar una modificación del decreto sin ser una maravilla eh la nueva regulación que se plantea en nafarroa yo creo que hay elementos

nafarroa han sido capaz qué son más diligentes que este gobierno

de aptitud cuál es el problema cuál es el problema

yo creo que ese es el problema mencionaba la portavoz del partido socialista la vacunación de los centros

el escenario de vacunación para nosotras también es un horizonte de esperanza

la vacunación de los centros residenciales y de las personas usuarias de centros residenciales es un horizonte por un lado de esperanza

muchas de las medidas de contención adoptadas se puedan relajar con casi carácter inmediato porque el bienestar de las personas no solo es el físico

que en muchos casos de la gestión ni se han tenido en cuenta ni se han respetado

junto a la esperanza también tenemos un miedo tenemos un miedo

que ese horizonte les sirva a ustedes para dar carpetazo a un debate necesario al debate sobre las condiciones en las que cuidamos a dieciocho mil quinientos personas en los centros residenciales de la comunidad autónoma vasca

por cierto hay una cuestión que conviene aclarar por enésima vez no hay un modelo no hay un modelo hay varios modelos al menos uno por cada herrialde

el de araba qué junto a una gestión directa pública convive un ámbito muy importante construido

no existe no existe un modelo existen varios modelos

y la previsible enésimo bloqueo de las propuestas de la oposición es que sobre un debate que afecta a

al cuidado de dieciocho mil quinientos personas los grupos

ni podemos proponer ni podemos opinar ni tan siquiera podemos preguntar eskerrik asko

evidentemente se adoptaron medidas en momentos muy complicados y el debate o el estudio

qué mejoras debemos de introducir en el mismo teniendo en cuenta

desde que apareció porque seguimos estando todavía dentro de la pandemia del covid diecinueve es necesaria y es evidente pero el compromiso de realizarlo

se recogió ya dentro del acuerdo de gobierno éramos conscientes ya en ese momento que evidentemente había que revisar ese modelo

para mejorar porque revisar para mejorar siempre es constructivo siempre es positivo y evidentemente que se va a hacer y se va a realizar pero no solo se va a realizar aquí dentro de nuestra comunidad autónoma vasca se va a realizar y se ha puesto en marcha

una ponencia para revisar en positivo en constructivo qué

residencial para mejorar a futuro es decir ese debate es que está ahí y ese trabajo está

y se está realizando se va a realizar aquí en nuestra comunidad autónoma es que de eso no me cabe ninguna duda porque revisar para mejorar siempre es positivo contamos con un buen modelo pero darle una vuelta hacer un estudio y tomar unas conclusiones para mejorar eso evidentemente teniendo en cuenta esta experiencia que nadie nos hubiéramos imaginado pero evidentemente la realidad nos la ha puesto encima de la mesa

con independencia de que se apruebe hoy aquí su enmienda transaccional

su enmienda transaccional en este pleno de eso no le quepa la menor duda señora gonzález y tampoco a usted señor rodriguez luego iniciativa confunden términos porque hablan por un lado de campañas de sensibilización cuando en realidad lo que están pidiendo

texto de todo lo que va después es que se le dé una formación a determinadas personas entonces confunden muchas veces campañas de sensibilización con formación confunden las competencias

entonces nosotros evidentemente que estamos de acuerdo en que se tiene que realizar esa revisión por supuesto que se va a realizar pues también estamos convencidos pero a nivel estatal porque es lógico que queramos y a nivel de comunidad autónoma es lógico que queramos mejorar para que

ese estudio de esa revisión pues adoptemos las medidas que nos permitan si algo

en un futuro pues estar muchísimo más fuertes y que evidentemente

mucho mejor hay compromisos asumidos termino y se van a cumplir

corresponde a la alta inspección garantizar el ejercicio del derecho subjetivo proclamado en el artículo dos de esta misma ley eta

a los servicios sociales comprobar la adecuación de los niveles de servicio o prestación ofrecidos por el sistema vasco de servicios sociales comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos

en relación con la planificación programación de los servicios sociales autorización e inspección de

verificar la adecuación de los conciertos y contratos de gestión de los servicios sociales a los criterios establecidos por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo orduan

de esta alta inspección y se vinculan al objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo a los servicios sociales como se concreta en la ley

en definitiva el cometido de la alta inspección se centra en la garantía de ese acceso efectivo de la ciudadanía a las prestaciones y servicios

a los que tiene derecho subjetivo de acceso en los términos definidos en el decreto de cartera de prestaciones y servicios

el impacto de la crisis del covid no está comprometiendo de manera significativa el acceso efectivo a los servicios y prestaciones de las personas que tienen derecho

que hablar de maltrato institucional sinceramente me parece una falta de respeto hacia todos y todas que luchan contra esta pandemia y para cuidar a los que más queremos me parece sinceramente una falta de respeto hablar de maltrato institucional

gracias señora presidenta miembros de la mesa miembros del gobierno

primero y segundo señorías la moción

es una moción ciertamente sobre el tema de prisiones es una moción sobre el tema de competencias es una moción sobre la administración pero sobre todo es una moción sobre transparencia transparencia

mire esta moción es por todos conocido proviene de una interpelación que le hice a la señora consejera

de gobernanza pública y autogobierno relativa al traspaso de los medios materiales y humanos para el ejercicio de las competencias relativas a la organización régimen y funcionamiento de los servicios penitenciarios lo que se suele conocer no es exacta

precisa la expresión pero lo que se suele conocer como el traspaso de prisiones por entendernos aquí hoy

este proceso que es un proceso de transferencia que es un proceso sobre todo de ajuste de lo que son los medios materiales los medios personales

pues ha sido un proceso que se ha llevado con total opacidad hay un borrador de acuerdo nos hemos ido enterando por la prensa yo no digo que no haya que tener una cierta discreción en ciertas cuestiones pero a mí lo que realmente como parlamentario me resulta muy llamativo es que se le dé siempre preferencia a filtraciones a los medios que nos tengamos que ir enterando de esto por los medios en lugar de enterarnos aquí en este parlamento

y que además es a la que va a afectar mayoritariamente o principalmente esta transferencia ha salido en la prensa pues que había un borrador de acuerdo ha salido en la prensa pues que había una fecha límite para el último día de este mes o del mes que viene perdón del mes de marzo ha salido en la prensa

han salido en la prensa mire el tema en primer lugar de la transferencia de lo que son las prisiones los medios materiales y personales para el ejercicio de estas competencias

compleja y delicada por muchos aspectos es compleja y es delicada les pongo en situación señorías en primer lugar el tema de funcionarios he leído también en la prensa que es la forma habitual de enterarnos de cuestiones que puedan afectar al gobierno

que de setecientos el número efectivo de funcionarios que en este momento

de los centros sitos en el país vasco en cuanto a los internos

del país vasco de los cuales la mitad seiscientos cincuenta setecientos aproximadamente están en tercer grado con lo cual formalmente en el centro todo el día

pues la mitad seiscientos setecientos también hay unos

les correspondería por su situación de arraigo por su situación personal y familiar estar en un centro del país vasco sobre todo el día que se produzca en futuro la transferencia pero que están en otros centros penitenciarios sobre todo

internos que están en lo que se conoce como el segundo grado y están en prisiones principalmente en palencia en cantabria etcétera el efecto inmediato de lo que implicaría la asunción de esa competencia más que de la competencia de la transferencia de los medios en sí es que a duplicar triplicar el número efectivo de la población penitenciaria en el país vasco ese es ese es el efecto principal y primordial que se va a producir

que se han discutido en este parlamento resoluciones y algún documento que se preparó en su día por parte del gobierno

es parece la desconfianza que se tiene de cara a los funcionarios que ejercen en los centros penitenciarios del país vasco miren los funcionarios que ejercen

muy importante de esas propuestas que hemos ido conociendo por cuentagotas en su momento y también a través de la prensa en su momento pues ahí lo que parecía

hacia estos funcionarios y sobre todo una confianza en que el famoso tercer sector iba a hacer un mejor trabajo de reinserción social en la práctica tiene toda la pinta de que

de completar este traspaso de medios materiales el efecto que va a tener secundario también va a ser el privatizar

en el tercer sector porque eso también es privatización ese es el efecto que va a tener ese es el efecto que va a tener pero este yo creo señorías

en mi opinión ese es otro debate el debate hoy es sobre la transparencia sobre la obligación de que un gobierno

a los parlamentarios para ejercer su trabajo y sobre todo sobre esta institución porque una cosa es que haya un gobierno que esté digamos sostenido por dos grupos que suman aritméticamente una mayoría absoluta

y por eso la propuesta que yo hice iba encaminada era una propuesta muy sencilla una propuesta muy sencilla simplemente era una propuesta que lo que decía es que en un plazo razonable ya que según la prensa nos hemos enterado de que ya están solo con la letra pequeña

lo único que se pide en la propuesta que yo hago a esta cámara hoy es que en veinte días que en veinte días

pero lo que yo pedía en esta propuesta es que el parlamento hoy la apoye para que el gobierno simplemente nos envíe la información de la que dispone simplemente sin entrar a valorar el aspecto relativo al modelo de prisiones sin entrar a valorar el aspecto relativo a de qué manera

solamente información yo solo he visto opacidad en todo este proceso lo digo con tristeza la verdad es que la mayoría absoluta el otro día dijo la señora gorrotxategi que es que se les ha subido la cabeza y andan como pollo sin cabeza yo la verdad es que

qué mal les ha sentado la mayoría absoluta pero sobre todo qué mal ha sentado para la función de control que debe ejercer este parlamento sobre esta cuestión es que vuelvo a insistir nos hemos tenido que ir enterando por la prensa yo acudí su momento ya lo dije

acudí a la lectura detenida de los presupuestos no había nada sobre esta cuestión acudí a la idea digo a lo mejor en la comisión de gobernanza nos hablan de esta cuestión tampoco acudí a los funcionarios tampoco

el tema de los niveles retributivos y dos el nivel de euskera las dos únicas cosas que al parecer han preocupado hasta ahora que sepamos ojalá supiéramos más pero como no nos lo quieren decir no lo sabemos

tampoco han tenido reuniones corteses todo el mundo efectivamente lo reconoce corteses y tal pero bueno

y esa es la propuesta que hacía el gobierno o mejor dicho esa es la enmienda a la totalidad que presenta el gobierno como suele ser habitual bueno

y ya si eso en su día que mande la información cuando esté completada la transferencia yo por eso lo que digo señorías

me lo pueden objetar si lo estiman conveniente yo les animo a todos los grupos sobre todo a los de la oposición que apoyen esta propuesta que voten a favor de ella porque es que es simplemente

instar al gobierno a que nos mande la información necesaria para hacer nuestro trabajo la información necesaria para hacer nuestro trabajo yo no vengo hoy a defender aquí ahora

centrar el debate en la cuestión relativa a la posición que tiene este parlamento que es una posición institucional muy importante y que desde el comienzo de esta legislatura está siendo

las propuestas que presentamos todos los grupos se ven en mayor o menor medida todas ellas enmendadas por el gobierno esto es normal esto es normal

es cierto es evidente la aritmética es así pero una cosa es sacar adelante propuestas en votaciones y otra cosa es obligación que debe tener el gobierno la obligación que debe tener el gobierno o que tiene el gobierno de hecho de proporcionar la información necesaria a los parlamentarios para el ejercicio

cosa que ahora mismo no están haciendo y es curioso porque este mismo grupo el grupo mayoritario en esta cámara el partido nacionalista vasco luego en el congreso le critica lo mismo muchas veces al grupo ahora ya porque están un poco medio apoyando no pero les critican mucho le ha criticado mucho eso al psoe le ha criticado eso mucho

pero siempre ha criticado eso en el congreso y sin embargo cuando les toca a ellos evidentemente pues

y además lo hacen con una firmeza tremenda desde luego esa política de oscurantismo por eso yo simplemente señorías pido aquí y ahora

podemos discutir qué cuáles son las propuestas alternativas que se han presentado hoy aquí en esta cámara cuál es la propuesta que ha presentado por ejemplo la propuesta del grupo elkarrekin podemos pues mire yo a lo mejor no estaba muy de acuerdo con la redacción que se dio

pero estaba dispuesto a apoyarla estaba dispuesto a que mi grupo votará a favor

simplemente porque también combinaba al gobierno a que presentara algo algo por lo menos un plan algo algo a esta cámara pero que lo presentara ya no

que lo mande ahora en un corto plazo de tiempo que lo mande ahora

con la base de la propuesta del grupo elkarrekin podemos

pero luego lo discutimos en esta cámara eso lo podemos discutir en esta cámara y ahí saldrá

la pluralidad y el pluralismo que está representado hoy en esta cámara pero es que ni siquiera eso ni siquiera eso la propuesta que hace el gobierno y que me parece no he llegado

entre los dos grupos que sustentan al gobierno y el grupo elkarrekin podemos parece que lo que hace es un poco ahondar en eso ahora nos lo explicarán los afectados vamos los responsables de ella y lo que hace simplemente es básicamente decir no que el gobierno continúe con su política de transparencia de verdad

con su política de transparencia de verdad y negociación de las competencias pendientes mire todo aquello que suene a instar al gobierno a que presente unos papeles determinados en un tiempo determinado es que esta ciertamente condenado al fracaso

simplemente lo que pedía era el apoyo y lo que pido ahora es el apoyo no para mí no para mi propuesta

lo pido para el papel institucional que corresponde a este parlamento como órgano de control del gobierno muchas gracias señorías eskerrik asko gordillo jauna

esta transferencia de medios de prisiones hace efectiva

a organización y al régimen de funcionamiento de los servicios penitenciarios que están previstos ya en el estatuto de autonomía en los artículos

está cumpliendo con algo que establece nuestro estatuto de autonomía por sí mismo consideramos que es algo bueno y que debe apoyarse pero es que además y enlazando con lo que estaba diciendo antes este debate esta transferencia es la que nos va a permitir

propio y distinto que y si me permiten voy a leer expresamente o literalmente lo que se recoge en los acuerdos del debate monográfico que se celebró el trece de marzo de dos mil diecinueve en esta cámara

que impulse prácticas restaurativas el régimen abierto en todas sus modalidades el segundo grado con salidas diarias de prisión o la libertad condicional

el acceso a los derechos sociales y en definitiva una gestión conforme a derechos humanos que sea inteligente y democrática basada en centros de

algunas de las cuales por ejemplo nos hablan de la necesidad de tener una relación más fluida más ágil entre las instituciones penitenciarias y las instituciones competentes en la gestión de las políticas públicas que permita definir protocolos e itinerarios sociosanitarios y sociales específicos

y desarrollar espacios de convivencia y reinserción social adecuadas y dirigidos a conseguir mejores procesos de integración y de reinserción social

en las cárceles vascas además también se recoge que el principio de igualdad de mujeres y hombres sea un eje vertebrador de las políticas

y la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal es decir hauxe dena

otro tipo de fundamentos y

que nosotros no compartimos y me estoy refiriendo ya no me refiero solamente

a cumplir con los traspasos necesarios para hacer cumplir el estatuto de autonomía me estoy refiriendo también sobre todo al modelo penitenciario que parece

de esta iniciativa en la que se dicen cosas por ejemplo como

se establecen dudas sobre la pretendida voluntad privatizadora externalizar los servicios al tercer sector y cosas así

también pensamos nosotras sí pensamos somos conscientes de que el traspaso de los medios personales y materiales

con ello solo no está todo hecho al contrario sabemos que tenemos un reto por delante que es muy grande pero y vuelvo a decir

de los centros penitenciarios esta transferencia nos da la oportunidad de pensar otro modelo penitenciario aquí en euskadi y eso es lo que

intentar aprobar en el parlamento cuando redactamos nuestra enmienda en esta enmienda sí

que en el parlamento presentara el plan del gobierno para poder hacer una valoración sobre el mismo y también

que los acuerdos las resoluciones adoptadas en el pleno monográfico el año pasado fueran la base del modelo penitenciario que fuera

del ejercicio de las funciones traspasadas

el partido nacionalista vasco y con el partido socialista hemos conseguido esta transaccional

estas necesidades básicas primero que se traiga el plan al parlamento se dice además en la transaccional que hemos firmado que será

exactamente dice una vez sustanciada la transferencia es decir entendemos que es de manera inmediata

inmediatamente se trae el plan el acuerdo a este parlamento y además también se reconoce que

en el pleno monográfico del año anterior y se acoge además un punto también

que el plan incluirá también mecanismos de seguimiento y de evaluación periódicos que puedan ser traídos a esta cámara a la comisión correspondiente y podamos valorar y hacer nuestras precisiones y valoraciones sobre el mismo

lo fundamental de nuestras pretensiones y por eso quería agradecer a los dos grupos esta disposición

llegar a un acuerdo amplio en una materia que yo creo que es fundamental en este país simplemente me gustaría terminar añadiendo una reflexión y es que askatasunaz aparte kartzela ezin da

eguerdi on guztioi hoy debatimos una moción sobre el traspaso de los medios materiales y humanos para el ejercicio de las competencias relativas a la organización régimen

una iniciativa sobre esta materia pero nunca de la mano del grupo populares vascos en este caso junto a ciudadanos la interpelación de la que viene esta moción

traspaso la consejera de gobernanza pública y autogobierno ya dio cumplida respuesta y no voy a repetir lo que ya dijo pero sí que me gustaría resaltar alguna cuestión y sobre todo

porque usted interpeló al gobierno sobre la forma pero en realidad quería información sobre el fondo cuestionando incluso la propia transferencia

corrige y promueve el debate y la toma de postura de esta cámara sobre y cito textualmente en qué condiciones en concreto espera asumir el traspaso de los medios personales y materiales para el ejercicio de las competencias relativas a la organización régimen y funcionamiento de los servicios penitenciarios

prevé la competencia de la comunidad autónoma del país vasco para la organización régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios y de reinserción social

las circunstancias que no voy a entrar a valorar y mencionar ahora que han impedido que se cumpliera

hubo que esperar a que hubiera el cambio de gobierno en españa para que se reuniera la comisión mixta de transferencias

fue posible que a finales del año dos mil dieciocho se desbloqueara y que por fin el gobierno vasco y el gobierno español

entre ellas la referente a centros penitenciarios esta manifiesta voluntad política no fue correspondida en el pasado por los gobiernos del partido popular

son treinta fichas sobre transferencias pendientes servicios que podemos asumir y otras que se descartan el acuerdo de gobernabilidad suscrito el pasado septiembre entre mi partido el partido socialista

y partido nacionalista vasco que se recoge en el programa de gobierno euskadi en marcha dos mil veinte dos mil veinticuatro

y ambos partidos nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente con el gobierno español para materializar las negociaciones en relación con las competencias pendientes materias y servicios susceptibles de ser transferidas entre los que se encuentran la gestión de centros penitenciarios según un cronograma que ha sido necesario actualizar debido a la afección de la pandemia de la covid hemeretzi y es que los socialistas

el cumplimiento íntegro del estatuto defendemos que se cumpla la ley en todas partes también con esta ley que además es un pacto entre vascos y de vascos con el resto de españa y es y debe ser y debe seguir siendo un instrumento útil para la ciudadanía no es una cuestión ni de agravios

a usted le preocupa y así lo manifestó en su interpelación que nunca se piense de qué manera se va a ejercer mejor de forma más eficiente una determinada competencia por parte de las administraciones y mire le voy a decir algo y es que la mayoría de la sociedad vasca eso lo tiene muy claro el euskobarómetro en dos mil dieciocho incluyó preguntas en relación a la opinión de la sociedad vasca sobre la transferencia de prisiones y una amplia mayoría la considera positiva

en la mayor eficacia de la gestión autonómica en su interpelación se refería usted a lo que ya se había hecho hasta ahora para definir un modelo penitenciario propio en euskadi y creo que lo hizo de pasada o quitándole importancia hoy lo ha vuelto a mencionar y mire estoy convencida

mejor la competencia cuando se reciba esa transferencia es necesario crucial tener un modelo penitenciario con unas líneas estratégicas así como una buena planificación que permitan tomar decisiones en materia de bienes materiales y bienes personales

deben partir de la voluntad mostrada por la comunidad política

en esta cámara una proposición no de ley que reclamaba una visión resocializadora del sistema penitenciario

que salieron del pleno monográfico del trece de marzo de dos mil diecinueve y que también se han mencionado y además en la legislatura pasada con la entonces viceconsejera de justicia y ahora compañera

era la realidad de nuestras cárceles cuáles sus necesidades y cuál el modelo que queríamos poner en marcha con las nuevas herramientas que íbamos a tener a nuestra disposición para ello se contó con la inestimable ayuda de expertos

es importante saber no solo lo que se va a recibir sino lo que se quiere

y se quiere para completar un modelo de gestión penitenciaria integral que trabaje para la reinserción social de las personas condenadas por cualquier delito y que quienes

asuman su responsabilidad y el daño causado por lo tanto desde hace más de diecisiete años la sociedad vasca reclama una clara orientación humanitaria a la política penal y penitenciaria en el terreno personal y material esta transferencia se concreta en el personal de instituciones penitenciarias que se integrará en la estructura de la administración de la comunidad autónoma vasca y en los bienes inmuebles correspondientes dice señor gordillo que con la transferencia se va a triplicar la población

que se va a dejar a los funcionarios para que gestionen el papeleo

o solo van a gestionar el papeleo como ya le dijo la sailburu garamendi tal y como está

serán respetados todos los derechos adquiridos de cualquier orden y naturaleza

y sí me gustaría destacar el compromiso que tienen esos funcionarios y funcionarias y cómo se han volcado en conseguir que quienes han delinquido cumplan las penas que les han sido impuestas por los juzgados y tribunales y puedan reinsertarse

y acoso y arriesgando su vida un recuerdo y reconocimiento

de secuestro y asesinato y es que el marco de actuación una vez se asuma la competencia está configurado por la ley orgánica general penitenciaria el reglamento penitenciario y el real decreto unocuatrocientos treinta y seis barra mil novecientos ochenta y cuatro de veinte de junio

tanto respecto a la disponibilidad de plazas para determinados presos información de los ingresos traslados clasificación permisos y otros datos que afecten a la situación penitenciaria de los internos de los establecimientos que gestionen en su ámbito territorial y

señala que la dirección general de instituciones penitenciarias y la administración penitenciaria de cada comunidad autónoma procederán conjuntamente a determinar las plazas óptimas y máximas de cumplimiento de penas que se transfieren

no hay improvisación no hay opacidad se sabe lo que se va a recibir y es que el proceso de traspasos en cuanto a su contenido es totalmente transparente y está perfectamente protocolizado pero tan importante como eso como saber lo que se va a recibir

a escasos días de haber interpelado en esta misma cámara la sailburu garamendi en torno al traspaso de prisiones

y en esa línea va a seguir y debe seguir mi intervención porque todo el proceso de traspaso de la competencia en materia de servicios penitenciarios fue profusamente explicado por la sailburu he de comenzar por algo indiscutible el compromiso político claro de este gobierno y de este grupo de dar cumplimiento íntegro al estatuto de gernika y alcanzar el autogobierno

pendientes de transferir algo que no pueden decir ustedes porque nos han dado sobradas muestras de su negativa al cumplimiento de una ley orgánica como es el estatuto de gernika ya que vuelve a traer este asunto a la cámara

sus compañeros del partido popular en el congreso pidieron la no transferencia a euskadi de la competencia de prisiones defendieron

negando el estatuto y negando a euskadi a que asuma las competencias pendientes y ahí nos va a tener siempre por cierto reclamaron la no transferencia de una competencia que estaba incluida en el denominado

actualmente hasta treinta y dos materias tenemos pendientes de traspaso afortunadamente contamos con un cronograma y con el compromiso de dos gobiernos de avanzar en su ejecución y dentro del primer paquete de competencias es donde se encuentra

en una negociación bilateral en la que se trabaja para alcanzar el objetivo de un acuerdo sobre los servicios y funciones que asumirá

en materia penitenciaria el marco legal en el que se trabaja es claro el referente siempre

donde se prevé la constitución de una comisión mixta de transferencias para ir labrando los consensos que nos lleven a ejercer nuestras competencias de la mejor manera y en las mejores condiciones para todo este proceso de traspasos disponemos de un amplio

que avala el cambio de titularidad de esta y otras competencias y que debe guiar el texto del acuerdo acuerdo en el que como ya le he dicho se está trabajando en reuniones técnicas y grupos de trabajo que están teniendo lugar

la del estado y nuestra administración en el seno de la mencionada comisión mixta de transferencias y en el que se contemplará lo que usted perfectamente conoce

tanto administrativa como económica de los centros penitenciarios ubicados en nuestra comunidad autónoma y también recogerá cuestiones como las obligaciones y contratos

no hablamos como intencionadamente lo hacen ustedes para enredar y confundir

penitenciaria hablamos de gestión de una gestión cercana que permita mejorar el funcionamiento de las prisiones y la resocialización

un acuerdo que instamos en el convencimiento de que era algo ya asumido al gobierno

a esta cámara nuestro gobierno lidera con pulso firme la consecución de un autogobierno completo así como la defensa del ya alcanzado ello supone lograr y garantizar un mayor bienestar para la ciudadanía vasca y como buenos gestores llevaremos a buen puerto tal propósito con la materialización de las transferencias pendientes entre ellas la que hoy nos trae la gestión de centros penitenciarios

y con las mejores condiciones técnicas eso es lo relevante estamos ante una materia compleja con muchas aristas y lo importante es seguir trabajando

y estén seguros que este gobierno y sus consejeros y consejeras no pararán hasta lograr todas las competencias que por ley nos corresponden

sea un ejecutivo desnortado y oscuro hablan y en concreto usted en sus últimas intervenciones de un gobierno agotado

evidentemente esa no es la realidad que vivimos en este país si no son sus anhelos tenemos un gobierno con principios sólidos y con unos compromisos claros para con su ciudadanía entre otras materias en autogobierno y en asumir todas aquellas competencias

tenemos un gobierno con impulso y fuerza suficiente para llevar a cabo la tarea tanto de conseguir la transferencia de las materias pendientes como la gestión eficaz y eficiente de dichas materias gestión cercana en todos los ámbitos redunda en el beneficio de la ciudadanía y tenemos un gobierno que sí además cuenta con una amplia mayoría en esta cámara pero que sin embargo desde la misma

por lograr consensos amplios y en la cuestión relativa a la transferencia de competencias en la gestión y funcionamiento de los centros penitenciarios radicados en euskadi

un envite a la línea de flotación de las negociaciones

al trabajo desarrollado en la comisión mixta de transferencias le interesa lo primero atacar el proceso negociador en el seno de dicha comisión y poner en tela de juicio

en las reuniones técnicas que se están celebrando con un calendario previsto y en un momento de relación fluida entre las dos partes gobierno vasco y gobierno español

todas y cada uno de los detalles de la transferencia y en su postura tienen un fin claro evitar que se pueda alcanzar ningún acuerdo entre ambos gobiernos en relación al ejercicio de las competencias que a euskadi le corresponden porque su política la de su partido sigue

a la del autogobierno no tiene ningún interés en que se cumpla lo acordado y lo aprobado hace más de cuarenta años en el estatuto

supongo que luego llegará su turno o el de su grupo de tratar o de cuestionar el modelo que se adopte para ejecutar dicha competencia corresponderá a la consejería de igualdad justicia y políticas sociales la competencia de desarrollar la nueva política pública en materia de organización régimen y funcionamiento de los servicios penitenciarios y las propuestas

en el pleno monográfico del trece de marzo de dos mil diecinueve serán la base el modelo penitenciario a implantar en euskadi y efectivamente ante este parlamento también se será transparente y claro en las medidas y en la planificación de llevar a cabo ese modelo hoy los compromisos que tenemos firmados son sólidos y no flaquean hay voluntad de negociación y hay voluntad de acuerdo y sobre todo señor gordillo

hasta ahora se han materializado otros traspasos en la pasada legislatura se llevaron a cabo transferencias en varias materias carreteras líneas ferroviarias que actualmente ya se gestionan de manera impecable por nuestra administración vasca y ahora se está realizando

para culminar otros traspasos como la de la gestión de centros penitenciarios

su gestión el funcionamiento la organización de bienes servicios contratos obligaciones en materia de prisiones

de política pública que además de basarse en las propuestas resultantes del pleno monográfico de la pasada legislatura seguirá los ejes claves

las personas la convivencia el autogobierno y los derechos humanos y todo ello señor gordillo con transparencia y claridad

al término de la ronda de intervenciones de esta ronda de intervenciones pedir un receso para poder terminar de firmar y suscribir y bueno y algunos flecos que quedan pendientes

buenos días señoras señores parlamentarios en vox igual que ha dicho la señora del pnv también somos claros y décimos lo mismo siempre aquí y en madrid

dicho esto la propuesta de hoy requiere hacer también un pequeño análisis de lo que está en juego

porque yo lo único que he oído es que pide claridad un análisis que es fundamental para entender la profundidad del asunto le adelanto al proponente que votaremos sí y lo haremos porque aunque creemos que es un grave error la transferencia de prisiones

relevante conocer los datos y qué se está pergeñando el señor urkullu pnv ha hecho de la necesidad virtud

han decidido echar por tierra la memoria y dignidad de las víctimas se tiende a hablar de la batalla del relato pero no es justo hablar en términos de dos relatos enfrentados no lo es efectivamente hay familias que deben de viajar horas para ver a los asesinos pero eso es incomparable con el paseo al cementerio para ver a un ser querido al que se juzgó y asesinó con el beneplácito de gente

y es que la estrategia vasca de prisiones tiene dos vertientes la que se debate hoy la transferencia de prisiones por parte del pnv

son dos caras de la misma moneda el primer momento

lo reconocía en una anterior comparecencia el señor

los presos a casa y luego para que se puedan entender los dos partidos

tenemos ahí el programa hitzeman lo leí ayer detenidamente durante la noche antes de venir aquí además es público para todos todos pueden acceder a él y además

saben cuántas veces se menciona la palabra arrepentimiento en el programa para presos etarras ninguna se habla de reflexión autocrítica expresión eufemística que no es ni por asomo sinónimo de arrepentimiento

si como tantas veces hacen toman como referencia moral los derechos humanos unos derechos cuya aplicación es más notable para unos que para otros

solo les haré una pregunta se han puesto en la piel de una víctima que ha perdido a su padre o a su hijo han pensado por un momento qué sentirían si les dicen que tienen que convivir y socializar

no dejaremos de denunciar esta situación y de perseguir cada caso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

eh bilduk duen posizioa se ha mencionado en más de una ocasión el monográfico que se celebró en marzo de dos mil diecinueve se han traído algunas de las cuestiones que allí se debatieron y que se

y yo quiero poner sobre la mesa una posición que trajo el pp entonces la primera propuesta de resolución que no salió aprobada claro está y decían corresponde al gobierno de españa y al gobierno vasco en el seno de la comisión mixta de transferencias acordar la transferencia de las competencias relativas

y añade cuando se den las condiciones sociales oportunas que en este momento todavía no existen en nuestra comunidad autónoma

a que ratifique estas palabras que nerea llanos hace dos años defendió en esta misma

para ustedes hace dos años no existían las condiciones para que se trajera esta competencia a la comunidad autónoma vasca y hoy tiene la oportunidad de decir si usted cree que sí

o puede ratificarse en que todavía no tenemos estas condiciones

no tiene mayoría de edad para ejercer la competencia de penitenciario para completar el estatuto y

decidir su futuro en este caso en el ámbito de la ejecución penitenciaria y de la ejecución penal

la sensación de que efectivamente usted con esta iniciativa

a sembrar la duda y a poner palos en las ruedas horregatik erabaki genuen zuzenketarik ez sartzea joko horretan ez genuelako

que tenemos expectativas importantes en torno a la gestión alternativa de la política penitenciaria que somos ambiciosos en el respeto de los derechos de las personas presas y es cierto

y algunas de las resoluciones y tal vez en el segundo turno

se podía haber adelantado trabajo ustedes parece ser que han

van a traernos un plan que podía haber ya avanzado en algunos ámbitos baina eh bilduk esan behar duena da etxeko lanak